gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días miembros del gobierno señor lehendakari

de estos presupuestos vamos a votar contra unos presupuestos que son unos presupuestos de los partidos viejos y para los partidos viejos

elaborados y pactados por los partidos viejos fundamentalmente para defender sus intereses partidarios y para blindar sus ámbitos de poder que obvian efectivamente las necesidades reales de los ciudadanos y los intereses

de espaldas a los ciudadanos son unos presupuestos que consolidan recortes y ajustes que consolidan el disparatado

y que sustentan un proyecto político nacionalista en este punto no podemos obviar la defensa que el lehendakari ha venido haciendo durante el primer año de legislatura respecto de la necesidad de construir una nación vasca en europa

o realizar en próximos años una consulta evidentemente esto no podemos obviarlo y es una razón también poderosa para votar en contra de estos presupuestos que como digo sustentan ese proyecto político

son unos presupuestos de unos partidos políticos que anteponen sus intereses partidarios a los intereses reales de la ciudadanía son unos presupuestos de unos partidos políticos que prefieren recortar

una vez más se opta por lo más fácil cuadrar las cuentas en lugar de impulsar las reformas que euskadi necesita estos presupuestos

la educación la sanidad la protección social

los centros tecnológicos las investigaciones estratégicas el empleo y el apoyo al comercio y en general recortan todas aquellas partidas indispensables para salir de la crisis y poner la base de un futuro económico mejor para todos estos presupuestos además mantienen

y el mismo gasto superfluo de siempre embajadas apoyo al euskera en el sur de francia delegaciones de e i te be en navarra y en el sur de francia y todos los gastos que provoca un entramado institucional

y una administración excesivamente voluminosa esto efectivamente no se toca esto se salvaguarda y por lo tanto aquellos partidos políticos que van a votar a favor de estos presupuestos o que incluso se van a abstener van a dar a todo esto que acabo de señalar estos presupuestos claramente la protección social y el estado del bienestar consolidan un entramado institucional que upyd sigue pretendiendo modificar

un proyecto político nacionalista que nosotros queremos impedir que se lleve a cabo en este sentido el partido nacionalista vasco sin renunciar a ninguno de sus postulados ve cómo el partido popular y el partido socialista de euskadi

y al proyecto político que sustentan ni siquiera han logrado dulcificar el proyecto del partido nacionalista vasco sencilla y llanamente

todos los departamentos reducen su presupuesto respecto a dos mil doce a pesar de algunas enmiendas aprobadas en comisión lo cierto es que

se recorta la cooperación al desarrollo en más de treinta millónes de euros lo cual supone una reducción del treinta por ciento respecto a dos mil doce lo que contraviene históricos compromisos de este parlamento y la propia ley de cooperación al desarrollo se mantienen las delegaciones vascas en el exterior presupuestadas en más de dos coma seis millónes de euros cuando ni su existencia están justificadas la representación política exterior de euskadi ya está cubierta por las embajadas de españa y la de expansión e internacionalización

mientras que es el instituto etxepare el organismo encargado del fomento y la extensión del euskera fuera de nuestras fronteras el lehendakari además mostró en pleno su deseo de que las delegaciones vascas en el exterior sean realmente embajadas y de extenderlas a otros países en un futuro lo que muestra las intenciones del gobierno vasco por lo tanto aquellos partidos políticos que voten a favor o se abstengan de estos presupuestos avalarán también todo esto se mantienen asignaciones presupuestarias para el fomento del euskera en el sur de francia el fondo de innovación

los sesenta y cinco millónes de euros se reduce considerablemente para el próximo ejercicio se reduce en un gran porcentaje se produce una reducción generalizada en todos los programas y partidas relacionadas con la innovación y la competitividad

la tecnología la investigación estratégica el turismo el comercio interior y la internacionalización entre otros el gobierno vasco con estos presupuestos presupuesta para la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda una cuantía que resultará insuficiente teniendo en cuenta lo ejecutado en dos mil doce y la previsión de cierre para dos mil trece presupuesta por lo tanto para la renta de garantía de ingresos y la prestación

claramente insuficiente y más allá de que sea obligatorio para el gobierno o debería serlo atender todas las solicitudes su obligación también es presupuestar

riguroso y la nuestra por lo tanto exigirle que lo sea y no lo es tampoco en este caso en absoluto el gobierno vasco

claramente insuficiente veinte coma cinco millónes de euros no se hace el esfuerzo necesario en estos presupuestos en los programas de becas

investigación no se hace el esfuerzo necesario en infraestructuras y obras en centros educativos no se hace el esfuerzo necesario en apoyar el trilingüismo las partidas relacionadas con el impulso y la normalización lingüística sin embargo siguen siendo cuantías muy elevadas no compartimos que se mantengan cuantías presupuestadas tan extraordinarias

recortes sociales y se reducen partidas de impulso

económica efectivamente puesto que no hay dinero para todo es cuestión de prioridades y este gobierno parece preferir euskaldunizar a los ciudadanos antes que rescatarlos de la crisis durante dos mil catorce

más de cien millónes de euros a la promoción del euskera el presupuesto de e i te be aumenta respecto a dos mil trece de ciento diez millónes de euros

no solamente e i te be no se racionaliza ni se redimensiona sino que incluso incrementa su presupuesto y todo esto

mientras se convierte lo hemos visto durante este primer año en un instrumento al servicio del nacionalismo vasco además e i te be

sedes que son en nuestra opinión claramente innecesarias y por otro lado la deuda vasca se situará a final del próximo año en más de nueve mil

en dos mil catorce y es un dato interesante se destinará a pagar la deuda el doble que a la pobreza y todo esto en fin y mucho más que todo esto va a ser avalado

a la aprobación de estos presupuestos ya digo con su apoyo bien con su abstención todo esto y mucho más es lo que van a avalar con su posición política y con su voto por lo tanto el partido socialista de euskadi y el partido popular

han avalado ya todos los recortes y todos los ajustes recogidos en estos presupuestos el partido socialista de euskadi y el partido popular

además el mantenimiento del gasto superfluo identitario e innecesario que en otra época no tan lejana criticaron y además criticaron contundente el partido socialista de euskadi por lo tanto y el partido popular van a avalar también con su voto favorable o de abstención el proyecto político del partido nacionalista vasco

y oposición contundente al proyecto político del nacionalismo

el partido socialista de euskadi y el partido popular se pliega a los intereses del partido nacionalista vasco efectivamente ustedes

sin embargo no mueven un dedo para impulsar todas las reformas que euskadi necesita modernizarse apuestan más por lo tanto por la cosmética la publicidad y por la propaganda pero reformas y reformas de calado ninguna todo sigue básicamente como está nuevamente más recortes más ajustes pero ninguna reforma de calado como iré explicando brevemente porque sobre la materia ya nos hemos posicionado en muchas ocasiones en este parlamento lo cierto es que no se produce

ni lucha contundente contra el fraude fiscal ni traslado de las competencias fiscales al parlamento vasco ni reforma del entramado institucional ni reforma de la ley de territorios históricos ni reducción del sector societario todo aquello que hemos venido planteando incluso de la mano de algunos otros partidos políticos nada de esto se va a hacer todo esto se pospone se deja se dice que para más adelante pero lo cierto es que nada de esto se ha ya digo que solo maquillaje publicidad y propaganda y el partido popular y el partido socialista de euskadi le compran al partido nacionalista vasco todo esto en lugar de impulsar una de verdad al nacionalismo vasco le compran todo esto le compran todos los recortes y le compran que todo siga como está efectivamente

ciertamente tienen larga experiencia apaños sí clientelismo

es más incluso apropiación indebida de fondos públicos a mayor gloria de los intereses partidarios o los ayuntamientos amigos

tanto el partido nacionalista vasco como el partido socialista de euskadi como el partido popular clientelismo apaños y apropiación indebida

de sus intereses a mayor gloria de las localidades donde gobiernan o a mayor gloria de las localidades donde aspiran a gobernar esta la forma de hacer política del partido nacionalista vasco del partido socialista de euskadi y del partido popular clientelismo y apaños para defender

de los ciudadanos reformas por lo tanto y cambios de calado no pura cosmética y efectivamente el partido nacionalista vasco está feliz el gobierno vasco está feliz el señor lehendakari está feliz sin renunciar

tiene sus presupuestos y además una alfombra roja por la que transitar la alfombra roja que le han puesto el partido socialista de euskadi

oposición política de verdad en lugar de hacer oposición de verdad renuncian a sus principios a muchos de sus principios que han venido defendiendo todos estos años y terminan aplaudiendo con las orejas el proyecto político del partido nacionalista vasco en el fondo

esto que efectivamente va a suceder hoy esto de que el partido socialista de euskadi y el partido popular se pongan de acuerdo con el partido nacionalista vasco

el partido socialista de euskadi y el partido popular se negaron a impulsar una alternativa al nacionalismo vasco cuando gobernaron

y hoy en la oposición en lugar de ejercer de oposición se dedican a hacer la ola al partido

el partido socialista de euskadi y el partido popular terminan como siempre haciendo la ola al partido nacionalista vasco se conforman

se conforman con cuatro enmiendas con cuatro enmiendas se conforman ustedes cinco cinco me dice el señor damborenea
pero son cuatro son cuatro enmiendas son cuatro enmiendas

para sus ayuntamientos amigos para los lugares donde gobiernan o para los lugares donde aspiran a gobernar puro fraude político

han planteado en lugar de hacer oposición al partido nacionalista vasco se pliegan a sus intereses parece que no hay oposición en este parlamento más allá de unión progreso y democracia por lo tanto cuatro

cuatro millóncejos para defender sus intereses en lugar de plantear una alternativa el partido socialista de euskadi y el partido popular y efectivamente sigo con el partido socialista de euskadi y el partido popular han pasado de decir que querían ser alternativa al partido nacionalista vasco

el botín con él en fin ni siquiera realmente han llegado a tanto ya digo cuatro enmiendas cuatro millóncejos lo cierto es que su papel ha sido más bien el de comparsas o simples palmeros algo que el partido nacionalista vasco por cierto ni siquiera

en el futuro al tiempo el siguiente paso quién sabe puede que sea presentarse en coalición

una coalición de partidos viejos conformada por el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular para

para que todo siga como está para impulsar más recortes sociales para impulsar más ajustes para defender sus propios intereses de partido en fin quizás deban ustedes pensárselo bien y en fin pensar esta opción que yo les planteo coalición electoral

partido popular únicamente les han diferenciado cuatro cinco enmiendas en fin pueden ponerse de acuerdo en todas las instituciones bien saben ustedes que el partido nacionalista vasco no se lo va agradecer pero eso es la posición política

el partido socialista de euskadi y el partido popular simples palmeros y comparsas de lo importante ya digo nada ni fortalecimiento del estado del bienestar ni reforma en profundidad del sistema tributario

ni traslado de las competencias fiscales al parlamento ni reforma del entramado institucional ni reforma de la lth ni reducción del sector público societario

estas cosas que son tan importantes para algunos partidos políticos son simples minucias que no deben interferir en la negociación presupuestaria en fin

pero seré breve en cuanto a la reforma del sistema tributario que ustedes han pactado

en esa reforma fiscal uno que esta ha llegado demasiado tarde y no tiene repercusión relevante en estos presupuestos y dos que no ha sido en absoluto lo suficientemente ambiciosa ni asegura que tengamos una fiscalidad común para el conjunto de los ciudadanos ni ha sido

a las rentas del trabajo ni se han impulsado todas las reformas fiscales necesarias ni las que se han tomado han sido todo lo progresivas que deberían haber sido tanto en lo que se refiere a las tarifas como se refiere a las deducciones en relación a la lucha contra el fraude fiscal durante años

tal como upyd ha venido reclamando de manera insistente la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de otras medidas
a las que se negó permanentemente a ver mesedez maneiro maneiro barkatu

la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de otras medidas a las que siempre se ha venido oponiendo el partido nacionalista vasco

de más recursos económicos que hubieran podido ser destinados a cubrir las necesidades reales de la sociedad vasca durante dos mil trece se ha acordado cierto

de lucha contra el fraude fiscal que será la encargada de elaborar un plan conjunto contra el fraude en el seno del órgano de coordinación tributaria pero

consideramos que es una medida insuficiente y en todo caso que todavía no se ha producido y podríamos preguntar también qué pasa con la interconexión en tiempo real de las bases de datos informáticas de las distintas haciendas para mejorar

del fraude fiscal se ha puesto ya en marcha cuándo se va a poner en marcha parece que asistimos a un cúmulo de promesas que no terminan en absoluto de

respecto al sector público societario siguen sin tomarse las medidas suficientes para racionalizar redimensionar o reducir drásticamente el sector público societario la administración paralela es decir los centenares de opacos entes fundaciones empresas públicas y empresas semipúblicas que siguen existiendo y por donde se nos van grandes cantidades de recursos públicos año sigue sin llevarse a cabo ni plantearse la necesaria reducción del número y la dimensión de los organismos públicos que conforman el voluminoso ineficiente y opaco sector público societario

para el redimensionamiento y la racionalización del sector público societario presentado por el gobierno vasco es puro maquillaje pura publicidad y pura

queda lejos de lo que debería hacerse y apenas supone reducción de gasto de hecho cómo vamos a esperar que este gobierno plantee un plan

los miembros del gobierno han venido repitiendo que el sector público societario no está sobredimensionado es imposible por lo tanto que presente un plan con esos objetivos y que lo ponga en marcha respecto al entramado institucional y la ley de territorios históricos no ni se plantean medidas concretas para reformar el entramado institucional vasco ni para reducir las duplicidades las ineficiencias y las desigualdades

la ley de territorios históricos de esto no hay absolutamente nada para reducir esas duplicidades esas ineficiencias esas desigualdades ese gasto superfluo solo tenemos una ponencia para estudiar el asunto

dos mil trece pura publicidad y propaganda aparentar que se hace algo cuando no se hace nada en absoluto el mantenimiento de todo este entramado por muy histórico que sea consume

que podrían destinarse a otras cuestiones más provechosas para los ciudadanos por lo tanto si las reformas anteriores se hubieran llevado a cabo tendríamos más recursos para elaborar los presupuestos que los ciudadanos necesitan porque

los recursos públicos a lo verdaderamente importante al fortalecimiento del estado del bienestar a la sanidad a la educación a la protección social

a ayudar a nuestras empresas y autónomos en lugar de destinarlos a mantener instituciones superfluas o entes inútiles se sigue haciendo estas medidas y reformas señaladas deberían acompañarse de otras para reducir el gasto superfluo innecesario e identitario

a apoyar el tejido productivo a los autónomos a las pequeñas empresas y aquellos que tienen capacidad de generar riqueza y puestos de trabajo por tanto ni se han impulsado las medidas necesarias para tener más recursos ni se han impulsado

ni se han elegido bien las prioridades de inversión de gasto todo esto es en nuestra opinión lo que se le tenía que haber exigido al partido nacionalista vasco y no se ha exigido nada de esto no se ha exigido se ha optado por no hacer oposición política contundente y así quedan las cosas como están un presupuesto que viene a ser un presupuesto como los anteriores pero que en este caso concreto además consolidan

y nuevos ajustes ya digo que nada de esto quieren impulsar ni el partido popular ni el partido nacionalista vasco ni el partido socialista de euskadi ni reforma fiscal ambiciosa

ni lucha contra el fraude fiscal ni reforma del entramado institucional ni reforma de la ley de territorios históricos ni adelgazamiento de la administración paralela creada

durante estos años en la práctica ninguno de ellos quiere hacer nada de esto todos ustedes quieren que esto siga como está van

no quieren cambiar nada en el fondo ciertamente son todos ustedes muy parecidos en el fondo nada de esto les preocupa a ustedes

ha quedado de manifiesto en este primer año de legislatura y así ha quedado de manifiesto también

y en las enmiendas que los diferentes grupos han planteado

solo les preocupan sus intereses les preocupa por lo tanto el cambio de cromos los apaños aprobar sus presupuestos aquí o allá o regar con fondos públicos a sus ayuntamientos amigos

se llama esto esto es por lo tanto lo importante para ustedes blindar sus intereses partidarios y proteger sus ámbitos de poder basta con observar las enmiendas que ustedes han presentado para ustedes la política debe ser esto chanchullos para mantener sus ámbitos de poder no es lo que nosotros pensamos que tiene que ser la política

un partido político que está en la oposición quien esté en la oposición y no va a hacer oposición creo que directamente sobra la oposición no es negociar cuatro enmiendas sino intentar cambiar realmente las cosas y ustedes han preferido otra vez recortar antes que impulsar las reformas necesarias anteponen sus propios intereses partidarios

de los ciudadanos el partido nacionalista vasco está feliz no solamente está feliz el partido nacionalista vasco está sobrado a nosotros nos daría vergüenza dejar de ser oposición para convertirnos en simples palmeros y meros comparsas del nacionalismo vasco

del año que el partido popular y el partido socialista de euskadi se han convertido en meros comparsas y en simples palmeros del nacionalismo vasco mientras ustedes les aplaudenellos financian en gipuzkoa humana a favor de la independencia y ustedes son cómplices de todo esto y de lo que venga después por no haber hecho oposición contundente a

esta es por lo tanto la verdad de los hechos en opinión de upyd el partido popular y el partido socialista de euskadi le han puesto una alfombra roja al partido

ni defender una alternativa al partido nacionalista vasco sino sencillamente asumir el rol de palmero defender una alternativa política tiene que ser algo más que pactar unas cuantas enmiendas para los ayuntamientos amigos enmiendas para irún para barakaldo para ermua para eibar para portugalete

e impulsar las reformas necesarias es lo que nosotros planteamos al partido nacionalista vasco hace unos meses y lo que le volvimos a plantear recientemente siempre estaremos dispuestos a negociar presupuestos pero

tienen que cambiar las cosas y tiene que cambiar la línea política del partido nacionalista vasco si no la cambian no pueden contar con nosotros y nuestra obligación por lo tanto cosa que otros no hacen es seguir ejerciendo de oposición
por todo esto y mucho más votaremos en contra de estos presupuestos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren

porque cuando los que dicen que hacen oposición contundente

el gobierno debe estar encantado porque es evidente que esa oposición tan contundente al gobierno

de los partidos de viejos con muchos años más que los que estamos aquí en fin en política

las justas y necesarias y mientras otros partidos tan nuevos usan las orejas para varias cosas al parecer nosotros las usamos para escuchar si al señor maneiro le sirven para más cosas

del multiuso que le da a sus orejas nosotros tenemos que decir que evidentemente este no es nuestro presupuesto y como no es nuestro presupuesto a diferencia de otras oposiciones contundentes hemos presentado nuestra alternativa a este presupuesto

más de seiscientos prácticamente el triple que la oposición contundente a la oposición

y que por lo visto se le ha olvidado defender hoy en este trámite algunas de esas enmiendas

dentro de la poca alternativa que había en un presupuesto prácticamente sin maniobra está reflejada en nuestras enmiendas que movían más de cuatrocientos millónes de euros sin hacer trampas como otros

no se puede hacer y que todos sabemos que no se puede hacer pero bueno en este parlamento cosas veremos y cosas seguiremos viendo no es nuestro presupuesto

repito y es un presupuesto que evidentemente hace seguidismo del proyecto de presupuesto que se nos presentó siete meses y hace seguidismo del presupuesto anterior del partido socialista y ese seguidismo se traduce en que en el año dos mil doce

de euros de la cuenta de la deuda que este año hemos tenido que pagar más de cuatrocientos millónes de euros de la cuenta de la deuda que el año que viene vamos a tener que pagar más de ochocientos millónes de la cuenta de la deuda que prácticamente es el diez por ciento del gasto de todo el presupuesto

o por lo menos nosotros así lo vemos que en esa dinámica no podemos seguir luego habrá quien prefiera como la oposición contundente

en el que cuando los ingresos son mayores que el presupuesto prorrogado bueno el control más o menos de este parlamento de ese dinero tiene cierta viabilidad y utilidad porque las partidas que están

es este año que estamos en la prórroga de un presupuesto

para cumplir esas partidas supuestamente previstas y que ni nosotros ni otros grupos sabemos exactamente dónde se está recortando o ajustando pese a que lo hemos preguntado desde luego nosotros sí otros no pero nosotros sí lo hemos preguntado y la respuesta del señor consejero

que en el año dos mil catorce que vamos a tener todavía un presupuesto inferior al de dos mil doce pese al incremento de las recaudaciones previstas es preferible tener un presupuesto ajustado a los ingresos y gastos para saber exactamente cómo se está ejecutando ese presupuesto

cumple con las directrices que debería de cumplir nosotros sabemos que la situación económica que tenemos

gran problema que tenemos es el empleo o la falta de empleo y cada vez más

llevamos una dinámica peor todavía porque cada vez somos menos cada vez somos más mayores cada vez hay menos ocupados y cada vez hay menos jóvenes y los jóvenes preparados se tienen que ir a trabajar fuera

no nos gusta esa situación intentamos corregirla y los dos acuerdos que hemos hecho

van en esa dirección el pacto fiscal iba en la dirección primero

y nuestro acuerdo fue intentar minimizar por lo menos que los que menos ingresos tengan no tengan que pagar más como se reflejaba en ese pacto y luego segundo algo que se les había olvidado a algunos era favorecer con políticas fiscales que para eso tenemos un concierto económico

o también el fortalecimiento propio de las empresas con la autofinanciación porque para eso tenemos un concierto económico que nos da capacidades para que nuestras empresas puedan competir mejor incluso en la autofinanciación cuando

está como está y ni las empresas ni los particulares pueden acceder en condiciones normales al crédito necesario o para crear empleo o para invertir

nosotros cuando hemos comprobado este presupuesto que repito no es el nuestro

yo por poner solo un ejemplo nosotros en el departamento de desarrollo económico y competitividad y lo incrementamos en más de treinta millónes de euros para planes de empleo etcétera

no es ni por una enmienda ni por cuatro ni por cincuenta nosotros el acuerdo que hemos hecho es al margen de ninguna enmienda y el pacto que hemos hecho es por cero enmiendas el pacto que nosotros hemos hecho con el gobierno vasco es un pacto sobre la ejecución del presupuesto

de que esto de los presupuestos el papel lo aguanta todo se aprueban tal día como hoy

y el gobierno vasco ya ha hecho cientos de modificaciones en ese presupuesto aprobado a finales de diciembre

como me puedo referir al anterior que hacía exactamente lo mismo y por lo tanto lo que se aprueba aquí

pero casi y por lo tanto nosotros lo que hemos pactado es la ejecución de ese presupuesto y en esa ejecución de ese presupuesto nosotros estimamos y el gobierno estima

y que hay que cumplirlos de verdad en la ejecución no sobre el papel en la ejecución y nosotros sí estamos dispuestos y sí le pedimos al gobierno que ajuste más el presupuesto y sí le pedimos al gobierno que disminuya los gastos y sí le pedimos al gobierno y le décimos además

o con emakunde o con ese programa que dirige el señor jonan fernández se puede ahorrar mucho dinero mucho más de lo que se ha aprobado en las enmiendas en el trámite

estas partidas suponen más del triple de lo que se ha aprobado en la comisión

también sabemos y el gobierno parece que está de acuerdo que como el principal problema que tenemos

las prioridades de este gobierno tienen que ir a favorecer la creación o mantenimiento de empleo por eso hemos hablando del plan de apoyo a la actividad emprendedora previsto en el ley y nunca llevado a efecto

o el nuevo plan de industrialización que es evidente que tenemos que tener cuando estamos viendo y comprobando cómo a pesar del concierto económico

pues hay muchas empresas vascas que prefieren invertir o crear empleo fuera del país vasco en vez de en el país vasco por lo tanto parece necesario y parece que el propio gobierno reconoce

que haga que seamos más competitivos y que empresas no solo vascas sino fuera del país vasco vengan a invertir aquí pues sería un cambio de tendencia que se produjo ya hace muchos años

hace ya muchos años que empresas vascas están invirtiendo fuera del país vasco también es evidente que uno de los problemas que tenemos de falta de competitividad es debido a la conflictividad laboral

se le exige y el gobierno dice que está dispuesto a cumplir que esa conflictividad laboral que tenemos que es la más alta de europa prácticamente un tercio

dos millónes de habitantes como somos en un país de más de cuarenta y cinco

y que evidentemente afecta y mucho a la competitividad de las empresas nosotros entendemos que en esta materia el gobierno vasco no puede estar mirando o poniéndose de perfil o diciendo que se arreglen sino lo que tiene que hacer es articular medidas y medios

se empiece a resolver porque si no vamos a tener un problema mayor en los próximos años por no hablar también del plan de desarrollo rural que evidentemente a nosotros

y mucho por eso nuestro acuerdo señor maneiro no es de enmiendas

nuestro acuerdo es sobre la ejecución del presupuesto nuestro acuerdo le exige al gobierno que recorte más y que ajuste más el gasto corriente igual está muy mal visto pero nosotros lo que entendemos es que o se hacen las cosas como hay que hacerlas o vamos a ir muy mal no pensamos que estamos aquí para que nos vaya mal sino que estamos aquí por lo menos los que

para intentar corregir lo que el gobierno hace mal apoyado o no por el partido socialista y como pensamos que sabemos hacer las cosas mejor le ofrecemos al gobierno que le ayudemos a hacerlo mejor por eso hemos firmado este acuerdo para ver si el gobierno este año que viene
mejora en la ejecución del presupuesto y podemos hablar el año que viene de otras cosas muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

no se asusten esto no es por la tarificación o por el tarifazo eléctrico que pretendían poner ayer las grandes empresas

de la era tecnológica a la era digital nuevamente tiene una explicación y es una explicación gráfica

sí los ricos cada vez más ricos y el resto cada vez más pobres en febrero de dos mil diez

el lema de la campaña decía esto solo lo arreglamos entre todos y se proponía o eso decían infundir optimismo colectivo en plena crisis económica pronto se supo que los cuatro millónes que habían constado la campaña habían sido aportados por la patronal de constructoras españolas

otras de las diecisiete corporaciones más poderosas del estado español entre ellas el bbva santander repsol endesa o telefónica los grandes responsables de la crisis aquellos que han amasado vergonzantes tasas de beneficio en plena debacle económica

mientras se ejecutan expedientes de regulación de empleo y desahucios pretendían vendernos la ficción de que todos remamos en el mismo barco uno de los impulsores de la iniciativa guillermo de la dehesa pidió en la presentación de la campaña

y a la vez hizo una llamada a la sociedad civil para salir de la crisis

a otra cosa más autóctona que se dice por aquí de primar el valor del pacto del acuerdo entre diferentes porque eso es lo que este gobierno viene señalando como principal virtud

quedaran guardadas en un cajón para que primara el pacto no se sabe muy bien sobre qué es lo que en esta cámara vamos a ver hoy aquí

para comprobar que cada vez cuesta más distinguir quién es quién

que diariamente se aprueban en este parlamento para entender quienes estamos pagando la irresponsabilidad y la avaricia de los que realmente mandan por encima incluso

hoy el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular nos lanzan y avalan una propuesta presupuestaria que insiste en las políticas del ultraliberalismo europeo que insisten en definitiva

a la élite bancaria y empresarial que tan representados y tan a gusto y así lo han dicho ellos mismos se sienten

porque no nos engañemos existen dos clases o colectivos de personas con objetivos opuestos y en función

en torno a estas dos clases de personas o colectivos se produce un choque de modelos una confrontación de modelos

una clase de personas la mayoría trabajadora o en busca de empleo que debe pagar alquiler o hipoteca que paga impuestos altos en proporción a sus ingresos que depende de la sanidad y la educación pública y que tiene el exiguo colchón

y por otra parte existe una minoría que vive de las rentas y del trabajo de la mayoría que amontona dinero en plena crisis aunque la provocaran ellos

y que no necesita ayudas sociales porque los gobernantes de turno le regalan ayudas mucho más cuantiosas y jugosas cuando no les perdonan sus deudas o lo subvencionan directamente y este conflicto de intereses no se lo inventa euskal herria bildu ni siquiera llega a la conclusión por primera vez euskal herria bildu en la sociedad este conflicto de intereses es tanto o más viejo de que la historia se llama lucha de clases y ustedes han elegido defender a la minoría poderosa

y humillada ustedes señores del partido nacionalista vasco del partido socialista de euskadi y del partido popular

de la mayoría de la ciudadanía y para nosotros y nosotras para las gentes de euskal herria bildu la apuesta es clara en ese choque de trenes en esa confrontación de modelos

una canción y eso es lo que pretendemos trasladar a la ciudadanía tanto hoy como lo hicimos en el debate del pasado nueve de diciembre

a través de la defensa de las enmiendas parciales que hoy mantenemos para votación en esta cámara porque creemos que dichas enmiendas que empezaré a detallar a continuación son un ejemplo de hacía dónde debiera virar

de los que menos tienen y más sufren las consecuencias de la crisis aldez aurretik nabarmendu nahiko nuke gure taldeak

aukera gaurdanik landuz y mientras decidimos si llegamos a un acuerdo propio entorno al cupo entre diputaciones y gobierno vasco

ese cambio de rumbo necesario para romper con las políticas económicas que nos imponen y sufrimos hemos realizado una serie de enmiendas con partidas de reducción de gasto y con partidas

y de la misma manera que queremos acabar con los privilegios debemos dejar de sostener unos gastos que son profundamente injustos en unos casos e innecesarios en otros

planteamos suprimir las partidas destinadas al tav que es quien se lo está llevando todo en detrimento a las ayudas

viéndose las pérdidas en la calidad de vida de los ciudadanos por eso planteamos suprimir la partida destinada al tren de alta velocidad que en estos presupuestos aparece con trescientos setenta millónes de euros

económica y medioambiental un despilfarro de dinero público que nos priva de invertir en personas y sus necesidades y no el cemento el señor egibar en el anterior debate presupuestario

infantil que euskal herria bildu solicitara que kutxabank invirtiera o aportara seiscientos millónes de euros a través del presupuesto para promover un cambio estratégico del tejido industrial en nuestro país

estos días hemos podido leer el gobierno se plantea que quizás haya que pedirle seiscientos millónes de euros a kutxabank para invertirlos en el nudo de bergara del famoso trazado de la y vasca

y que además nos priva a los ciudadanos y ciudadanas de disponer de más recursos para tener una vida digna cuál es la lógica es muy fácil la lógica de la defensa de unos intereses frente a otros intereses es la lógica

a la mayoría de la ciudadanía euskal herria bildu propone que se aumente las partidas en ayuda de emergencia social

propone que se aumente la renta de garantía de ingresos en sesenta y cinco millónes para llegar a los cuatrocientos y tampoco es caprichosa

y propone que se aumente el complemento la ayuda de prestación de complemento para la vivienda en cuatro millónes y medio de euros más para llegar a los cincuenta y cinco

y no son ustedes quienes están arriba realmente

y es necesario dentro de su lógica acometer la demolición de eso que se ha dado en llamar el estado del bienestar ese sistema de protección social es por tanto una diana clara

que la protección contra el desempleo por ejemplo aparezca claramente recogida en la declaración de los derechos humanos por lo visto un derecho humano que ese sí es papel mojado

como digo de las clases dominantes es sencilla y muy efectiva consiste en sembrar la duda y llegado el caso señalar y digo señalar socialmente a los perceptores de ayudas sociales para que sea aceptable el recorte de las prestaciones y el destino de esas cantidades a negocios como el tav que amplíen los beneficios de unos pocos los de siempre

un consejero de su gobierno señor lehendakari el señor aburto recordando quizás a su antecesora en el cargo la señora gema zabaleta del partido socialista de euskadi se sumaba de forma deliberada o no

a una estrategia que consiste en señalar socialmente a los perceptores de la renta de garantía de ingresos porque señalaba que había que obligarles a prestar servicios comunitarios

porque esa medida sí que me recuerda a corea del norte que es uno de los recursos que suele utilizar para intentar desprestigiar las posiciones de eh bildu esa maniobra de obligar

una labor por una percepción de una ayuda social que es un derecho en todo caso y por eso digo que quiero creer que no es de forma deliberada

con lo que señalaba la vicepresidenta del gobierno de españa la señora sáez de santamaría cuando ofrecía datos falsos sobre el fraude de las prestaciones sociales

el mensaje que se traslada y que usted contribuye a trasladar señor aburto es que la clase trabajadora que la mayoría de quienes perciben esas ayudas sociales tiene

cuando la realidad es la contraria es la élite dirigente la que se lucra a costa de los recursos públicos por eso presentamos estas enmiendas porque sus políticas sociales

se lo dice la estadística año tras año cuando tienen que ver aumentadas sus partidas mediante ampliación de gasto para poder hacer frente a las demandas que los ayuntamientos les hacen para cubrir por ejemplo las ayudas de emergencia social

y porque no son los presupuestos de un gobierno al que le preocupe la existencia de cientos de miles de ciudadanos en situación de pobreza y unas cifras escandalosas de desempleo usted señor aburto también nuevamente y perdone la fijación en este caso ya veo que no le molesta yo también me alegro porque no es nada personal pero usted señalaba que estos presupuestos

sabe que si la cifra de desempleados aumenta y la percepción por desempleo que cobran se va agotando

o de posibles perceptores de la renta de garantía de ingresos y si usted lo que hace es endurecer las condiciones de acceso si usted lo que hace es poner cada vez más trabas y más condiciones como la de los treinta meses o como la de no contar con patrimonio alguno aunque sea raquítico y sea la octava parte de algún pajar

de no sé qué lugar lo que está haciendo es dejar fuera del sistema a un montón de ciudadanos y ciudadanas y todo ese eslogan de las pertsonak helburu de las personas

del sistema fuera de la protección social a decenas de miles de personas y se lo vamos a repetir una y otra vez tantas como sean necesario las ayudas sociales

son un derecho que nadie debe restringir si de verdad queremos hacer gala de eso en la que la mayoría de la cámara y parece ser que a excepción de eh bildu

la de ser verdaderos demócratas perol en cualquier caso esa estrategia de acaparación del dinero público en los bolsillos de unos pocos

diseñada y pensada para actuar en todos los campos también en el de los sueldos y también

y así se contemplan atacar y deslegitimar el sistema de protección social pero también apuntan hacia el entramado público y este presupuesto no lo evita privatizar lo público y ponerlo en manos privadas es un requisito fundamental para completar ese trasvase de millónes hacia esa minoría que nos maneja y por eso probablemente se caracteriza

se dice que ganan mucho y que viven bien en comparación con otras personas que trabajan en precario o no pueden encontrar empleo

anterior de los empleados de lo público es neutralizar la solidaridad de otros trabajadores a la hora de recortar salarios o reducir plantillas probablemente a los tres partido por igual al pnv al pse y al pp

les hemos oído hacer una competición en torno a quién es el mayor valedor y defensor del autogobierno sin embargo hemos visto como

se lleva a la práctica la concepción real de ese autogobierno porque aquí lo que vemos es un presupuesto donde se renuncia a decidir

qué clase de autogobierno es ese que no puede decidir sobre el sueldo de sus propios asalariados de sus propios trabajadores se dice que es por la imposición

a veces tenemos dudas no sabemos si es también de motu propio señor erkoreka y para tener esa percepción nos

cuando señalaba en la presentación de los presupuestos algo como esto y

luke aurrekontuaren zifrak nabarmen aldatzen direla probablemente usted ahí no se trabó

salarios públicos ahí sí entiéndanme bien porque esta es una transposición de una frase que decía benito juarez el decía una expresión que yo no se la quiero imputar a ustedes porque además lo hace en un contexto que es latinoamérica donde ese palabra tiene otro significado

que así no entenderán en ningún caso como una ofensa porque ya les digo que no es mi voluntad él decía malditos yo no lo diré pero benito juárez decía mal de aquellos que de palabra defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan

o bajar los sueldos de los trabajadores públicos pero lo hacen para cuadrar presupuestos mal de aquellos

mal de aquellos que dicen que van a frenar la destrucción de empleo en euskadi y cuando se es empleador destruyen puestos de trabajo a diario

han decidido destruir empleo público por eso euskal herria bildu ha propuesto una partida dotada con ciento cuarenta y ocho millónes

y también hemos propuesto aumentar en cincuenta y siete millónes y medio

y la creación de nuevos puestos de trabajo también en el sistema público de pensiones han encontrado quienes realmente dominan

auspiciadas por los bancos privados y ante esa lógica de recorte de las pensiones proponemos un sistema propio de pensiones y mientras eso no sea una realidad y nuestra voluntad

como digo mientras no sea una realidad ese sistema propio de pensiones respetar al menos las condiciones de vida y capacidad adquisitiva de nuestros mayores de los y las pensionistas

a través de enmienda la creación de un fondo de ocho millónes de euros para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las personas pensionistas de igual manera en sanidad

exigimos unas condiciones laborares dignas en el personal de osakidetza

encubiertos en no sustituciones y amortizaciones de plazas debemos fortalecer la estructura del sistema sanitario público por eso proponemos aumentar en ochenta millónes de euros

proponemos dieciséis millónes de euros para garantizar a todas las personas el derecho a la protección y a la atención sanitaria proponemos treinta y ocho millónes para comenzar el proceso de integración de la clínica

que compartimos sobre cuál ha sido la lógica de aceptación de los presupuestos a la hora de premiar a unos municipios por el mero cálculo electoral

solo así podemos encontrar lógica y sentido a que mientras una comarca como la de tolosaaldea una de esas comarcas sanitarias sigue sin contar con un centro público de referencia y se tienen que buscar vía concertación y por tanto apuesta por lo privado

se decide incluir en los presupuestos la generación de otro hospital en una zona que ya cuenta con uno por ejemplo eibar y mendaro solo esa lógica

con un nuevo presupuesto si se aceptaran las enmiendas asentado en bases entiendo que radicalmente diferentes al que ustedes traen hoy aquí a esta cámara señores del partido nacionalista vasco y con el apoyo o pacto o acuerdo del partido socialista de euskadi y del partido popular podríamos dar respuesta a las necesidades que realmente la mayoría de la ciudadanía de este país porque os hemos dicho en más ocasiones y se lo volvemos a reiterar hoy aquí

es vital que empecemos a caminar en una dirección contraria a la que nos imponen desde madrid y bruselas que hagamos camino en la soberanía y por la soberanía día a día creando instrumentos propios y al servicio de la ciudadanía y ese camino hacia la soberanía como fórmula de supervivencia para nuestro pueblo

se sustancia también en acciones concretas en un plan de acción concreta diez acciones coherentes con las enmiendas que hemos mantenido para debate en esta sesión

neurri eraginkorrak hartu behar dira eta iruzurrari tinko egin aurre apostemos por el carácter estratégico del primer sector iniciando

y permite romper con los circuitos de las transnacionales berrikuntzarako plana proposatzen dugu kooperatiba eta enpresa txikientzat euskal herria marka bultzatzeko

sendotzeko lidergo publikotik sostengamos los servicios públicos y la protección social efectiva es fundamental que nos dotemos de más recursos como señalaba para la cobertura de las ayudas de emergencia social y de la renta de garantía de ingresos y en lo que se refiere a la enseñanza pensamos que debemos aumentar las partidas como también he señalado en cinco cuestiones estratégicas ocho millónes para hacer frente a los recursos que se están dando en educación para empezar a elaborar una ley sobre el sistema educativo propio

como espacios naturales de actividad económica desarrollo y vida por ello es necesario que apostemos por una vertebración del país que ponga en valor lo cercano lo natural

que convierte a nuestro país a euskal herria en un páramo demográfico sostenido únicamente en el volumen poblacional de las tres grandes urbes

direla arlo guztietan hagamos pues una puesta clara a favor del reparto del empleo

socialmente equilibrada es aquella que sabe articular políticas e instrumentos para el reparto del empleo gizarte segurantzaren eskuduntza eta kudeaketa aldarrikatzen ditugu

señorías estaremos empezando a romper con aquellos que nos hipotecan el presente y nos secuestran el futuro solo así con un presupuesto diferente y una agenda política que nos sirva de guía hacia otro modelo de país y sociedad diferente al que actualmente padecemos y nos imponen estaremos siendo realmente útiles como políticos y políticas a la sociedad y pasaremos a ser parte de la solución y no parte del problema está probablemente en nuestras manos en la mano de todos y todas construyamos algo más digno más justo más libre y más igualitario

si vuelve a caer en saco roto nuevamente nuestra mano tendida para avanzar hacia un nuevo modelo económico y social hacia una construcción de país que sea realmente justa y equilibrada

que seguir manteniendo viva una reflexión que hace un joven de barakaldo en la actualidad imputado en la audiencia nacional un joven extraño porque tiene ochenta y dos años y se llama periko solabarria

zaharrak eta gazteak aipatzen esan dituzu en euskadi hay sitio para todos hay sitio para todas y para todas las personas que pensamos y trabajamos por euskadi que vivimos en euskadi no las

upyd que lo que hacen es usar y manipular euskadi con objetivos en otros sitios pensando en pescar votos

aterako euskadi necesita un compromiso de responsabilidad conjunta de todas y todos los agentes políticos implicados

comenzó este año con el acuerdo firmado entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco al que represento en el grupo parlamentario el grupo parlamentario al que representamos alderdi politikoen erantzukizun konpromisoekin

aurrekontuen proiektua egiterakoan los presupuestos que hoy debatimos y que hoy votaremos se elaboraron por el gobierno considerando y teniendo en cuenta también el acuerdo firmado entre el pnv

barne produktu gordina apurtxo bat hazteko aurrikuspenak la existencia de presupuestos aprobados para el año dos mil catorce permite adecuar las políticas públicas

a la situación económica real permite gestionar con corrección las finanzas públicas autonómicas añade seguridad jurídica y económica

institucional en lo económico y en lo presupuestario que se percibe por los agentes económicos y sociales y por la sociedad vasca en general como

zuek politika egiteko daukazuen bidea puro postureo pura teatralización puro espectáculo

una sociedad de castas esan duzu matute jauna

no es castas ni de clases ni de castas

y yo su grupo parlamentario y el nuestro sus miembros sus personas las personas que ustedes representan y las nuestras perteneceríamos a la misma esa sería nuestra voluntad y esa es la realidad ustedes intentan

pero la realidad no es esa ustedes son los que pretenden diferenciar unas unos

los que persiguen el bien y los que no persiguen quienes representan al pueblo y quienes no sé a quienes representamos esa es la sociedad que ustedes pretenden construir

eta zuek zer edo gu edo inor ez sueldo de los salarios sueldo de los salariados

no he hecho oposición a la oposición porque en ese caso me hubiera hecho oposición a mí mismo y no ha sido el caso en absoluto lo que he hecho ha sido explicar las razones por las cuales no apoyamos estos presupuestos y recordar evidentemente aunque algunos pretendan disimular

se acaben aprobando y quiénes son los responsables de que estos presupuestos plagados de recortes y ajustes y claramente injustos se terminen aprobando evidentemente el partido nacionalista vasco en primer lugar pero también el partido socialista de euskadi que no ha intervenido todavía como para disimular y el partido popular que no han hecho oposición

nacionalista vasco esto es lo que he hecho yo en mi primera intervención recordar cuáles son los argumentos para votar en contra de estos presupuestos y evidentemente señalar políticamente quiénes son los responsables porque el partido nacionalista vasco no hubiera podido aprobar estos presupuestos con sus escaños son también ustedes responsables y ustedes son responsables de que estos presupuestos

y de que el partido nacionalista vasco se mantenga tan feliz como ahora mismo les estamos observando en sus escaños evidentemente ellos siguen adelante con su proyecto político y se encuentran con que la oposición que antes representaban

y el partido popular ha dejado absolutamente de existir señor damborenea en nuestra opinión hacer oposición política

estos presupuestos no son nuestros yo creo que hacer oposición política es mucho más que eso

votar en contra de estos presupuestos y plantear una alternativa verdadera al gobierno vasco que representa el partido nacionalista vasco y exigir a este gobierno que cambie las políticas y que lleve a cabo las reformas necesarias y ustedes absolutamente pasar esta posibilidad de plantear estas reformas que al menos en opinión de upyd siguen siendo absolutamente indispensables pero claro cómo va a plantear una alternativa política el partido popular

a decir que no había mucha alternativa en relación a estos presupuestos qué se puede esperar de un partido político que dice que efectivamente no había mucha alternativa para cambiar las cosas evidentemente ninguna y por ello mismo

al parecer de estos grupos tratar de impulsar una reforma fiscal más progresiva más justa

esto no es hacer oposición esto no es

o luchar más y mejor contra el fraude fiscal o proponer la reforma del entramado institucional y de la ley de territorios históricos o reducir drásticamente el sector público societario en nuestra opinión eso es presentar una alternativa política más allá de presentar una serie de enmiendas para beneficiar

sus ámbitos de poder eso no es presentar una alternativa eso es acompañar en definitiva al partido

vasco ya digo que el partido socialista de euskadi ni siquiera ha intervenido como para disimular cuando todos sabemos que estos presupuestos son tanto del partido socialista de euskadi como

lo que hemos hecho para tratar de presentar una alternativa con nuestro escaño pues efectivamente presentarle al gobierno vasco un documento con veintidós propuestas concretas más allá de las enmiendas parciales casi doscientos cincuenta que hemos planteado una alternativa

hojas que le entregamos al consejero y en lo que nosotros pensábamos que debía basarse cualquier tipo de negociación un documento con veintidós propuestas para cambiar

e impulsar las reformas necesarias medidas concretas para el redimensionamiento y racionalización del sector institucional

reducción drástica del sector público societario redimensionamiento y racionalización del ente público e i te be apuesta decidida por las políticas activas de empleo

el comercio etcétera consignación de las cantidades reales que se prevén gastar en la renta de garantía de ingresos en la prestación complementaria de vivienda en las ayudas de emergencia social

el fortalecimiento del gasto social y el impulso de la actividad económica sobre cuestiones superfluas identitarias

aumento de las partidas destinadas a la educación en todos sus niveles en fin

apoyo al modelo trilingüe apoyo a la vivienda en alquiler aumento de las partidas

el documento que nosotros entregamos al gobierno vasco esto es para nosotros negociar señora gorospe claro que nosotros queremos negociar la política se basa en dialogar

a todo lo que diga el partido nacionalista vasco efectivamente nosotros no somos como los demás nosotros sobre esto queríamos negociar cuál fue la respuesta del gobierno a este documento presentado por upyd ahora usted dice que ustedes están siempre dispuestos a dialogar cero la respuesta fue cero

la correspondiente enmienda a la totalidad y presentar

que aquí cabemos todos salvo upyd y nos acusa de defender los intereses de españa es decir

todos los que no nos sumamos a los intereses del partido nacionalista vasco según usted estamos de más me parece ciertamente vergonzoso que usted nos sitúe

todo lo que hemos planteado en este documento son reformas y propuestas a realizar en euskadi y para los ciudadanos vascos todas ellas sin excepción propuestas de cambio

en euskadi para beneficiar no los intereses de los partidos políticos viejos no para defender sus ámbitos de poder sino para defender los intereses de los ciudadanos por lo tanto compromiso compartido sí

pero para cambiar las cosas a otro tipo de compromiso compartido a otro tipo de consenso nosotros no nos vamos a sumar por lo tanto en fin

en contra de estos presupuestos las enmiendas ya fueron defendidas en su momento las enmiendas el gobierno las conoce perfectamente

el resto de grupos pretendemos con estas casi doscientos cincuenta enmiendas fortalecer

garantizar el necesario gasto social financiar suficientemente las ayudas de emergencia social

el trilingüismo la educación la sanidad la innovación la cooperación al desarrollo el apoyo al turismo el apoyo al comercio la internacionalización de nuestras empresas el emprendimiento la infraestructuras y obras

y el empleo y un largo etcétera y puesto que hay que priorizar efectivamente planteamos presupuestarias en aquello que consideramos que es menos importante cuando no directamente superfluo esta es por lo tanto la alternativa que presenta

seguimos siendo coherentes seguimos manteniendo los mismos principios estas son

presenta a la sociedad vasca reformas a realizar aquí para beneficio del conjunto de la sociedad ustedes únicamente quieren el consenso para que todo siga igual para beneficiarse ustedes nosotros no
en ese tipo de acuerdos y en ese tipo de consensos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

señor maneiro parece que le molesta que le diga que hace oposición a la oposición pero es que usted sale aquí y solo habla del partido popular

su afiliación en el partido popular por mucho que se empeñe usted en decirnos lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer entre otras cosas porque como le ha dicho el señor matute coinciden ustedes en bastantes cosas

y a lo mejor van en coalición en las siguientes elecciones juntos porque coinciden en tantas cosas

en fin ese es su problema no es el nuestro

usted no ha presentado ninguna alternativa ha presentado doscientos enmiendas que no es una alternativa nada y su discurso de alternativa era la política fiscal y el fraude que hoy no estamos discutiendo eso y la lth que hoy tampoco la estamos discutiendo esa ha sido la excusa

que le vamos a hacer a lo mejor usted a cambio de esas cosas

así que ya le digo yo que es malo es mucho peor de lo que usted dice pero no se ha enterado

de los demás grupos al representante de bildu

yo le tengo que reconocer al señor matute que tiene su ideología que evidentemente hace ya muchos años que lo hablamos y que no compartimos en absoluto ya le dije que los trotskos en los setenta tenían su aquel

dos mil catorce pues parece que ha quedado un poco desfasado

pero por la propia historia por la propia historia yo solo le voy a decir una cosa el sistema que usted nos propone

ha funcionado en muchos países y se ha caracterizado lo común en todos ellos

queriendo huir de esos países esos dirigentes matando a la gente que quería huir de esos países y lo siguen haciendo

que a los ciudadanos afectados por esos paraísos se les mataba por querer huir del paraíso en esos países que usted nos propone

todos tienen pena de muerte sí sí en esos países que usted nos propone

sigue queriendo salir de esos países en algunos hoy se están muriendo de hambre

es necesario para gastos militares eso que usted tanto critica de los demás y sin embargo en esos países que usted critica tanto estos países europeos

no quieren venir de otros sitios quieren venir de otros sitios usted después de la experiencia de los últimos ochenta años de lo que ustedes nos están proponiendo no son capaces de sacar ninguna conclusión y por cierto su alternativa al presupuesto tampoco existe sus discursos ideológicos su alternativa no existe su enmienda al tren de alta velocidad

es una enmienda al ingreso ustedes lo que proponen es que no dispongamos de los trescientos setenta millónes de euros porque evidentemente si no son para el tav no son para nada y no vienen para nada y no vienen nunca y por lo tanto cuando usted dice no y nosotros queremos gastarnos doscientos millónes en no sé qué es mentira porque usted sabe que no dispone de ese dinero que la comunidad autónoma no dispone de ese dinero su alternativa no es real

su discurso es ideológico yo se lo admito no lo comparto en absoluto me parece que sería lo peor que nos pudiera pasar a los vascos en el siglo veintiuno que alguien nos pretenda retrotraer a lo peor del siglo veinte que

nosotros evidentemente no estamos de acuerdo y además no estamos de acuerdo con algunas medidas de copago por ejemplo en carreteras que plantean ustedes allí donde gobiernan con lo cual tienen sus contradicciones en esto del copago porque claro el copago no para unas cosas pero sí cuando lo pone bildu

y tanto a upyd decirle que nosotros sí hemos presentado una alternativa real basada en las seiscientos enmiendas parciales pero que también reconocemos y lo dijimos desde el principio que el margen de maniobra de un gobierno que se tiene que gastar más de ochocientos millónes de euros que es prácticamente el diez por ciento del presupuesto en pagar la deuda

sí queremos que a los vascos nos vaya mejor y nosotros sí queremos que el país vasco

por las medidas del gobierno del partido popular y de mariano rajoy y además queremos que el país vasco se enganche cuanto antes y en primera posición porque queremos

en crear empleo en toda españa y nosotros estamos dispuestos a ayudarle al gobierno en eso podíamos hacer algo tan fácil como decir que votamos en contra del presupuesto porque se recortan determinados gastos sociales o porque se invierte poco que es por ejemplo lo que hace el partido nacionalista vasco en madrid

recortan algunos derechos sociales este gobierno invierte todavía mucho menos

y recorta muchos más gastos sociales pero nosotros entendemos que hay que priorizar y nosotros entendemos que o salvamos y le damos la vuelta a las cuentas que tenemos o este país no va a tener solución y nos van a tener que intervenir y no queremos eso y por eso nosotros estamos

no cuando hay poco dinero sino cuando no hay dinero y sabemos que además molesta mucho tener que gastarse el dinero en pagar la deuda generada por unos y por otros por los dos pero repito nosotros estamos dispuestos a ayudarles a darle la vuelta a esa situación

un país vasco una comunidad autónoma competitiva en todos los aspectos y en todos los sentidos y esta es una forma

un partido político viejo nosotros como partido tenemos veinticuatro años no sé si eso es muy viejo o muy poco desde luego es una política

un poco novedosa porque lo fácil hubiera sido decir no a este presupuesto no es el nuestro

pero no lo vamos a hacer y no lo hemos hecho y el acuerdo que hemos firmado evidentemente lo vamos a cumplir siempre y cuando ustedes en la ejecución presupuestaria lo cumplan y yo sin más quiero desearles a todos una feliz navidad

que no tengo duda que con las medidas de mariano rajoy lo tendremos todos muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

señora gorospe bienvenida al neolenguaje está bien que hable de postureo está muy bien así quizás entienda por qué dije el otro día que la actitud del gobierno era procrastinadora que también es

le invito y le conmino a que mire lo que significa procrastinar y ser procrastinador y así verá lo que pienso de la actitud de este gobierno

acusa a alguien de postureo lo más racional sería prestar indiferencia no enfadarse con lo que es una mera escenificación falsa o exageración

se ha puesto encolerizada parecía la cólera de dios parecía lope de aguirre si me perdona pero

lo que hace usted y lo que hago yo y lo que hace cualquiera tiene un punto de teatralización y

nos podía deparar a cada uno de nosotros y nosotras una suerte de papel que puede no gustarnos

más allá de eso le diré por qué le ha parecido tan duro en esta intervención o postureo teatralización

claro nosotros lo que vemos es que hay sesenta y tres mil familias en este país que no tienen ningún tipo de ingreso ningún tipo de recurso

que están en situación de desempleo y lo que estos presupuestos les ofrecen es que sigan en situación de desempleo o que acepten contratos más precarios contratos con salarios más bajos

la renta de garantía de ingresos para poder subsistir y lo que vemos es que este gobierno sigue manteniendo raquíticos como bien señalaba el representante del partido popular porque algún sacrificio hay que hacer

sitúa en la línea de acción preferente de sus políticas la buena relación con kutxabank la misma kutxabank en la que ustedes

tienen una responsabilidad directa en hacia dónde está yendo y hacia dónde está privatizando y por qué no decirlo

y ustedes no lo están evitando y ustedes lo que están haciendo seguramente es alegrarse de que kutxabank

el dinero que les niega a los ciudadanos y ciudadanas de este país cuando les desahucia se lo está dando a los lobbies empresariales y eso a ustedes le parece bien y nosotros tenemos que salir aquí a denunciarlo por mucho que les parezca teatralización postureo o lo que quieran nosotros lo que creemos es que ustedes son procrastinadores en toda regla es decir que prefieren no hacer nada

porque esa es la casta de la que hablaba yo no digo que esto sea la india y sea una sociedad de castas digo que hay una casta diligente y la llamo casta porque quiero utilizar un término peyorativo hacia ellos porque me merecen el mayor de los desprecios

y lo que me parece en todo caso preocupante y yo sé diferenciar lo personal de lo político lo que me parece de absolutamente preocupante es que este gobierno se sitúe de perfil se ponga de lado

de desarrollo económico que no le toque mediar entre las empresas y los trabajadores sino hacer de árbitro lo que le toca es ponerse del lado

las consecuencias de la crisis y por eso digo que este es un país con clases y me atrevo a mantenerlo

cómo se puede ser clase media en un lugar donde no hay clases o es que han desaparecido se han volatilizado lo único que ha volatilizado en todo caso la llamada clase media

al señor damborenea que nos ha hecho aquí una lectura sobre lo que puedan ser mis ascendientes ideológicos dentro del marxismo no ha ido del todo atinado pero en cualquier caso le alabo

la primera que el discurso de euskal herria bildu no va dirigido solo a las gentes de izquierda o a las gentes soberanistas de este país nosotros nos estamos dirigiendo a la mayoría honrada de este país y no me cabe duda que entre la mayoría honrada habrá votantes del

no me cabe ninguna duda pero ante el expolio que se está haciendo en este país

la que no entiende como normal y natural que dentro de eso que llaman la concertación y la colaboración público privada se esté detrayendo dinero de sus bolsillos para enriquecer a las empresas de siempre

o de cualquier otra cuestión que no entiende como lógico y natural cómo hay determinados políticos y determinados dirigentes de determinados partidos políticos que pegan un salto casi

desde su escaño en el parlamento o en el gobierno a presidir el consejo de administración de una gran empresa con evidentes intereses

pero en cualquier caso sí le diré también que cuando usted hablaba de la no existencia de clases y hablaba de que todos en todo caso perteneceríamos a la misma y una vez hecha

aludiendo al señor damborenea pues le citaré a ernest mandel que era un pensador marxista y este sí trotskista probablemente todos seamos de la misma clase pero lo que nos diferencia a ustedes y a nosotros es el grado de conciencia sobre lo que somos y sobre lo que queremos en la clase en sí y la clase para sí no se asusten si no están

en cualquier caso pues esto lo tomamos con pildorillas poco a poco

nosotros somos clase para sí trabajamos para nuestra clase igual ustedes son clase trabajadora y están trabajando para la clase que les oprime eso sí sería hacérselo mirar

nos señala que no hacemos planteamientos realistas yo solo le voy a situar dos elementos y nos habla de gipuzkoa sabíamos que nos iba a hablar de gipuzkoa esta vez he venido

pero yo le voy a citar algunas cosas que hemos hecho en gipuzkoa que a ustedes no les han debido de parecer del todo mal porque han decidido abstenerse en ese presupuesto y no tirarlo para atrás que se podían haber hecho en este presupuesto y que a lo mejor

hubiera sido menos molesta para lo que entienden que es una defensa justa de los intereses de este país según su visión por ejemplo en gipuzkoa se ha apostado porque no pierdan poder adquisitivo los trabajadores públicos y hay una partida en presupuestos no existe en estos presupuestos por ejemplo

las trabajadoras no se vean sometidas a la reforma laboral y no vean bajar sus salarios

un colectivo que además son mujeres y como queremos una sociedad igualitaria o eso décimos pues tendremos que tener en cuenta que las mujeres a las que antes decía que se las iba a cuidar y empujar para que accedieran en términos de igualdad al mercado laboral y a todos los honores de la vida ahora se las condena nuevamente a casa y a la economía del cuidado que es invisible pues eso por ejemplo en gipuzkoa se ha hecho y no se hace tampoco en este gobierno pero también en gipuzkoa se ha hablado de las contrataciones públicas en la defensa de los derechos y condiciones laborales con cláusulas sociales y con reservas de mercado y eso no viene en este presupuesto y sí viene en el de gipuzkoa vean que se podían haber hecho cosas pero en cualquier caso

nos señalaba una cuestión que cómo podemos ponernos delante de la gente diciendo lo que décimos bueno pues nos ponemos delante de la gente y la verdad es que no nos sentimos solos porque hoy mismo creo que en la calle

porque es que resulta que la mayoría sindical vasca está haciendo una lectura de estos presupuestos que no difiere demasiado de la nuestra en cuanto a la critica y denuncia de la orientación liberal y de derechas que tienen estos presupuestos

la explicación de voto y no se vea terciando en este debate que entiendo pueda resultar incomodo toda vez que el propio representante del partido popular ya ha señalado que ha habido que hacer sacrificios y que los sacrificios cómo no han venido de la mano de seguir castigando a los que menos tienen de seguir castigando a los que se encuentran

pero termino con dos cuestiones usted hablaba de teatro de la teatralización de mi intervención yo no le voy a negar

pero no es porque decida denostar la acción de cada uno de sus señorías yo valoro el trabajo que hacen aunque muchas de las veces no coincida con él y así lo expresé

lo que pasa que no soy yo el que determina qué es teatro qué no es teatro y qué es útil y qué no es útil es que ayer mismo en madrid en el congreso de los diputados se votó la reforma energética se reformaron las pensiones la ley de cajas y la reforma de la administración local en un solo día

por desgracia para nosotros y nosotras y probablemente en eso podríamos coincidir las decisiones se están tomando allí y mientras tanto nos distraemos aquí y nosotros lo que les estamos diciendo

para empoderarnos para articular políticas que nos doten de herramientas propias que nos dejen de tener sometidos a lo que en madrid están decidiendo y ahí no vale jugar a pequeña no vale ponerle ni la txapela a los recortes ni jugar a pequeña en este famélico juego del mus que se traen con el partido popular

sobre lo qué es la sociedad actual y hacía donde nos lleva además de eso ustedes sabrán o ustedes pueden saber sino también está google y lo pueden buscar que en china

eso es lo que nos dicen cada vez que nos hablan de brotes verdes que nos vienen tiempos interesante que la cosa buena está por venir pues eso tiempos interesantes ese bienvenidos a tiempos interesantes en china se utiliza

de lo peor al más avieso de los enemigos besterik ez mila esker

porque usted habla a sus señorías como si los demás fuéramos sus señorías y usted sí por eso por el trato señoría matute

muy alta estima pero el problema no es ese el problema es que cuando baja aquí

el problema es que usted cuando baja aquí y cuando se refiere mire eso en el diccionario

miren en eso que deberían saber lo que usted está demostrando una y otra vez

somos sus compañeras y sus compañeros somos sus señorías como usted su señoría y lo que nos merecemos lo que nos merecemos

esa es su lógica de funcionamiento que si de verdad esa es su forma de funcionar tiene usted muy

va a tener usted muchas dificultades para salir a la calle y representar a las personas que probablemente no respetará porque nada nos puede demostrar

que quién no es capaz de respetar y considerar a sus compañeras y compañeros sean del partido que sean sea capaz

empatizar y representar al pueblo ez dut jarraituko

nos emplearemos a fondo para el acuerdo estamos dispuestas y dispuestos a hacer cesiones como creemos que el resto también tendrán que hacerlo porque el acuerdo que todas todos dejemos

en la gatera estas son las palabras con las que nuestro grupo parlamentario finalizó

diez meses estas son las palabras con las que nuestro grupo parlamentario finalizó un debate de fiscalidad hace tres meses y estas son las palabras que queremos recordar

el debate del presupuesto para el dos mil catorce que presenta el gobierno vasco porque esta es la vía porque esta

bien señorías tras un año completo de fracasos

y no por sus méritos sino porque los socialistas les hemos forzado a rectificar gracias a ello hemos podido pasar de unos presupuestos de recortes sociales a otros que garantizan los servicios públicos la protección social

porque estos no son nuestros presupuestos pero valoramos las mejoras sustanciales que por impulso nuestro se han introducido en este presupuesto

que salgan adelante es verdad que podía haber en ellos más ambición social

porque contaríamos entre otras cosas con más ayudas a la cooperación donde este gobierno no ha querido mover ni un solo euro

pero eso es lo que tiene que no gobierne la izquierda vasca sino la derecha nacionalista por mucho que el actual gobierno vasco trate de aparentar que es

es que es el gobierno del lehendakari urkullu y como se dice habitualmente

y que no podemos llegar a todo pero somos una oposición seria y consecuente no hacemos cosas raras ni las vamos a hacer no caemos en las soflamas revolucionarias

que no parece precisamente la reencarnación de ese mítico guerrillero y mucho menos insultamos insultamos a los parados pactando con el pnv subvencionar cadenas independentistas como si esto fuera una medida anticrisis porque señora gorospe

postureo y teatralización cuando oímos

pues aquí se hace lo mismo se teatraliza y después se pacta por detrás en otro sitio inmediatamente en contra de los intereses guipuzcoanos por cierto

la que se dedica a transformar la realidad para que los vascos podamos vivir mejor

y la huella se ve son novecientos millónes de euros más para luchar contra la crisis crear empleo y mantener derechos sociales para apoyar a los empresarios

de todo eso es de lo que nos hacemos responsables y con legítimo orgullo esa es la huella que deja la izquierda vasca de siempre este viejo partido señor maneiro

y es la que está representada en el partido socialista de euskadi un proyecto de país solvente es el que tiene este partido el único por cierto que hoy conoce de verdad la sociedad vasca un proyecto que por cierto el señor urkullu combatió a muerte desde la oposición

trató de erosionar con unos presupuestos socialmente regresivos

el proyecto que ahora ha tenido que asumir para poder empezar a gobernar de verdad

no por la reconversión socialdemócrata de su gobierno y del partido que lo sustenta

y asumir los objetivos políticos que hemos defendido los socialistas antes en el gobierno y ahora en la oposición así con un proyecto claro y definido es como se ejerce el liderazgo desde la oposición

a partir de hoy mismo que se han aprobado los presupuestos velando para que se cumplan a rajatabla

para que la comisión de lucha contra el fraude otra vez tenemos que hablar de ella se ponga a trabajar de verdad y las instituciones recuperemos

que todos los años se nos van por la alcantarilla del fraude fiscal

sea real y lo sea en breve plazo para que el gobierno vasco presente en breve el plan de incentivación económica y empleo para que el gasto social y de impulso a la economía

en el primer semestre pueda ser debatida y aprobada por este parlamento la ley municipal obedeciendo al mandato parlamentario y de acuerdo con el compromiso que ambos partidos

para acabar con duplicidades e ineficiencias del entramado institucional que suponen un enorme derroche de recursos públicos para hacer posible en definitiva que se cumpla en todos sus extremos el programa económico político social y fiscal que los socialistas hemos puesto en marcha como referencia de legislatura

con el menor respaldo concedido por la cámara vasca a unas cuentas públicas veintisiete escaños su grupo parlamentario esa es la escasa confianza que hoy por hoy despierta su gobierno en este parlamento y en sus manos está acrecentarla

y de sobre todo quienes lo están pasando muy mal

duros exigentes y también responsables

y no de lo que les preocupa a los nacionalistas de uno y otro signo y de que estos presupuestos se gestionen bien como ya dije en esta cámara le hemos dado

ya se lo anuncio todo lo que hace para garantizar a este país que usted cumple sus compromisos

comprende usted con toda seguridad nuestros recelos porque algún motivo nos ha dado para tenerlos

los socialistas todavía no acabamos de fiarnos de un gobierno que sigue teniendo su verdadero corazón a la derecha

con el partido socialista principalmente porque no le daban los números para entenderse con el partido popular muchas gracias eskerrik asko pastor jauna gai zerrenda agortuta